que está alineado la vez que complementa el plan berpiztu dos mil veinticuatro recoge dos ejes con cuatro componentes principales

estos son ámbitos estratégicos que persiguen posicionarnos y afianzar nuestra potencia en sectores de futuro que apalancarán el económico y social con intensa colaboración pública y público privada este eje consta de cuatro de ámbitos prioritarios

y salud y cuidado de las personas el segundo eje

debido a la llegada de recursos adicionales sectores o ámbitos de actuación en los que euskadi ya estaba trabajando en este caso también este eje consta de cuatro componentes primero calidad del hábitat humano digitalización e innovación de empresas y administraciones

de la vida como le decía el enfoque de por qué hemos optado en euskadi es el nuestro propio alineado con nuestros retos

de especialización inteligente reconocida por la propia unión europea recoge un planteamiento de colaboración

público privada tras un análisis planificado y estructurado una vez definido

nos corresponde alinearlos con los criterios establecidos por la unión europea en términos de plazos hitos indicadores de seguimiento etcétera

ya que los fondos están condicionados a su ejecución anual es un reto que desde el gobierno afrontamos con mucha responsabilidad y con espíritu colaborativo y como sabe y como usted también bien ha dicho el próximo día nueve de diciembre

el enfoque con más detalle en la comparecencia que he solicitado el objetivo es poder aprobar el veintinueve de diciembre este programa en consejo de gobierno y enviarlo al gobierno de españa para que lo incluya en la propuesta inicial

egun hauetako batean esan diozu sánchezi que no acaba de acostumbrarse a esta manera de proceder del presidente ba nik gauza bera

apremió a enviarlos cuanto antes enviamos una relación preliminar el mes de agosto siendo entonces un gobierno en funciones a partir de ese momento

de instituciones públicas en las que ustedes están representados también tanto municipios como también otras instituciones públicas como pueden ser los ejecutivos de las diputaciones forales que responden también en su caso ante los parlamentos forales

recibimos por lo tanto de instituciones públicas y también de colaboración público privada estamos recibiendo propuestas desde septiembre y estos proyectos tienen que encajar

el veintiséis de octubre hemos de analizar rigurosamente los ocho ámbitos prioritarios definidos y que ha explicado también

así como que supongan oportunidades de aceleración en ámbitos estratégicos además las propuestas tienen que ser factibles realizables en un plazo de tiempo muy determinado

desde una visión de país estamos manteniendo este proceso de contraste abierto para analizar las propuestas que estamos recibiendo de las instituciones confederaciones empresariales sindicatos cámaras de comercio entidades financieras cooperativas

universidades o asociaciones del tercer sector ese es el modelo de gobernanza colaborativa

lehendakari consejero señorías hace escasamente un mes en esta cámara este consejero explicaba las líneas estratégicas del departamento de turismo comercio

para el sostenimiento de la actividad económica y el sostenimiento de los empleos

la crisis sanitaria ya de reactivación económica también con programas y medidas en el plan de resistencia uno de los pilares o uno de los asuntos importantes eran los llamados bonos de consumo y yo me voy a referir

vaya por delante el reconocimiento de los socialistas vascos al sector del comercio por su colaboración en la lucha contra la expansión del covid diecinueve adoptando y adaptando sus locales a los protocolos sanitarios

esos mismos locales a las medidas de aforo normativas también higiénicas haciendo en definitiva de los comercios lugares seguros

comercio el pasado cinco de octubre se publicó en el boletín oficial del país vasco la orden que regulaba

el bono comercio fundamentalmente con un objetivo era el de incentivar y estimular el consumo en los ámbitos del comercio local y del comercio comarcal

a nuestro modo de ver son dos valores primero porque responde al diagnóstico realizado del sector del comercio vasco nos encontramos durante esta crisis sanitaria con un sector el comercial el veintiuno por ciento de las personas

trabajadoras afectadas por un erte pertenecen al ámbito del comercio

de las ventas en el segundo trimestre de este mismo año

tiene un peso en la economía vasca de casi el once por ciento del producto interior bruto y además representa el quince coma seis por ciento de los empleos totales de euskadi

diagnóstico del sector y también tiene otro valor a nuestro modo de ver muy importante y es que se basa en el acuerdo porque parte de un acuerdo con el propio sector comercial parte de además para su ejecución y desarrollo de un acuerdo también interinstitucional

en el ecuador de esa implantación del bono de comercio queríamos los socialistas vascos preguntarle consejero qué datos tiene usted qué balance hace de esa implantación del bono de comercio y sobre todo porque queda un mes para la finalización de esa campaña

y son unas fechas importantes para el consumo de la ciudadanía vasca y también importantes para la actividad comercial gracias eskerrik asko corcuera

egun on buenos días efectivamente la campaña de estímulo al consumo euskadi bono denda forma parte de un acuerdo pionero entre

y se enmarca dentro del plan de resistencia del departamento de turismo comercio y consumo

revitalizar uno de los sectores más castigados por la crisis así como contribuir al consumo también de las familias pues bien con los datos actualizados a fecha de ayer de los quinientos mil bonos emitidos por valor de cinco millónes

tres millónes de euros estamos hablando de que en estos momentos ya se ha generado un impacto superior a nueve millónes de euros y que esperamos alcanzar los más de quince millónes

del número de canjes en otros para poder redistribuirlos y permítame también hacer una reflexión respecto al consumo responsable en un día como hoy el black friday

un importante negocio está claro que el comercio local debe adaptarse a un escenario que está cambiando ya que desde la pandemia

y pago y consumidores más conectados entendemos que la digitalización antes era necesaria y ahora es imprescindible y desde el departamento estamos apoyando y ayudando al comercio

pero al margen del grado de digitalización el problema es que el pequeño comercio no se enfrenta en igualdad de condiciones a las grandes plataformas principalmente en lo que se refiere a tributación el papel del comercio y de las grandes plataformas en nuestra sociedad nos atañe a todos a las administraciones desde luego que debemos establecer un marco regulatorio pero que trasciende al gobierno de un país

ámbito mundial y no se trata de contraponer un negocio a otro comercio un tipo de comercio a otro tipo de comercio las grandes plataformas digitales son parte del presente

que tengan una tributación justa que respeten los derechos de los trabajadores especialmente los sindicales y que contribuyan a fomentar el pequeño

de nuestro territorio en este sentido yo creo que es positivo el reciente acuerdo

que ha sido apoyada por la mayoría de los grupos de esta cámara excepto el trío de colón

esta misma semana o de las negociaciones que hay de más de ciento treinta países en la oce y entendemos que

nosotros como consumidores no podemos quejarnos de que el comercio

determinarán la sociedad que queremos construir y en días como hoy más que nunca incidimos en que el consumo debe ser responsable y los consumidores deben conocer sus derechos si no planificamos nuestras compras si nos dejamos llevar por el ruido por las grandes ofertas si ignoramos nuestros derechos

lo que generamos son devoluciones excesivo movimiento de paquetería y de transporte y eso no es sostenible

hay que tener en cuenta que las decisiones que parecen individuales tienen consecuencias colectivas

en definitiva apuesta por el comercio local consumo responsable e informado por parte de los consumidores y valoración positiva de las medidas de apoyo al consumo aún quedan más de ciento cincuenta mil bonos de comercio que pueden ser utilizados en los establecimientos de euskadi para apoyar ese comercio local
y contribuir al desarrollo de nuestra economía muchas gracias eskerrik asko

lo incluido en la citada declaración de emergencia climática en materia de desarrollo económico eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzuteko

sí pero sin embargo a pesar de todo se sigue invirtiendo dinero público en gas

no lo cree la agencia internacional de la energía que ya en el informe de dos mil veinte apuesta por energías renovables y además nos está diciendo también que los precios de la energía solar tienen ahora precios récord de tres céntimos de euro por kilovatio hora mientras que la de gas se sitúa

céntimos es decir no es más barata tampoco

precisamente están apuntando hacia una transición energética basada en las energías renovables y si nos fijamos también en el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética que está

también en el artículo ocho se asume la necesidad de acabar con el gas y con el petróleo

y prohíbe expresamente la exploración la investigación y la explotación de hidrocarburos en territorio nacional

qué va a pasar o vamos a tener que ir corriendo a madrid a decir que por favor que este artículo no se apruebe como se ha hecho con el impuesto del diesel lo principal y lo más importante es que lo que no se puede hacer es utilizar el cambio climático el discurso del cambio climático

cuando se están dedicando fondos europeos o se quieren dedicar fondos europeos a petronor por ejemplo o cuando se emplea dinero público para la extracción y la

o cuando se elimina el impuesto al diesel por eso yo creo

y que se deje de invertir en hidrocarburos que destruyen el planeta y que ponen además en riesgo la salud de todas nosotras eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora gorrotxategi comparto plenamente sus deseos

ahora de la noche a la mañana son factibles mire vamos a orientar la transición a la economía verde como una oportunidad para el desarrollo socioeconómico y del empleo

la construcción de una euskadi más verde así mismo los nuevos planes de ciencia tecnología e innovación el plan de prevención y residuos de euskadi

en los que estamos trabajando contemplan la transición energética como una palanca de desarrollo socioeconómico

y contrastamos nuestro programa de gobierno con su programa electoral la coincidencia es evidente la transición energética transición energética

es un objetivo de país por el que merece la pena trabajar juntos cumplir estos objetivos energético climáticos está al servicio del desarrollo socio económico sostenible repito de la noche a la mañana mire

y le diré que el nuevo impuesto al diesel podría ocasionar un perjuicio directo al sector de la automoción básico para la industria vasca vamos a avanzar en la transformación progresiva

y la renovación de los vehículos más antiguos y más contaminantes

aplicar un nuevo impuesto al diesel en este momento y de forma inmediata pone en riesgo miles de puestos de trabajo nuestro modelo de desarrollo sostenible armoniza los objetivos energéticos y medioambientales que compartimos

y son posibles y así lo estamos demostrando eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera carlos iturgaiz angulo

hacía posible con su voto la aprobación en el congreso de la ley celaá una ley aprobada por un único diputado de margen lo que dice mucho de la nula voluntad de acuerdo y consenso una ley que arrincona a los centros concertados y lamina los de educación especial

un cúmulo de despropósitos que el pnv ha hecho suyos en los centros concertados usted lo sabe estudia la mitad del alumnado vasco

por eso se apresuró su gobierno a decir que la ley

nulo en euskadi vamos que buscarán cómo incumplirla

los perjuicios para alumnos y familias de una ley que el pnv ha apoyado en el congreso de los diputados eta hori da arazoa lehendakari jauna euskal ikasleen

lehendakari jauna yo le pregunto cómo se incumple la legislación básica qué pasará si dentro de tres meses cambian de opinión o si sus socios socialistas piden una aplicación estricta de la ley

qué pasará en septiembre con los centros de educación diferenciada y sus miles de alumnos en euskadi todos sabemos por qué dicen que no aplicarán la ley desde el gobierno vasco porque no les gusta

y de nuevo en la votación definitiva en el congreso y nosotros desde el grupo popular

vamos a darles también ocasión de pedirlo desde esta cámara con la proposición no de ley

la pregunta es cómo valora el impacto de la ley celaá en euskadi lehendakari jauna eskerrik asko iturgaiz jauna

besteak baino hobeagoa ez dela horrexegatik esta ley es un ataque es un ataque

es un ataque a la educación concertada es un ataque a la lengua española pero además es aberrante

especial y yo creo además que con la

aprobando en madrid esta ley y en cambio aquí no cumpliéndola no queriéndola cumplir porque dicen claramente

línea ustedes aprueban para valencia o lugo o para guadalajara lo que esperan incumplir aquí en el país vasco dicen sí en madrid con el gobierno sánchez iglesias y con bildu y ponen cara de chicos buenos aquí

con esta ley yo le quiero decir que en el fondo a ustedes señor lehendakari no les gusta la ley celaá

que usted mismo ha dicho como no le gustó el plan anticovid de sánchez en la primera ola

la señora mendia cuando le llamó desleal a usted señor lehendakari sí pregúnteselo a la señora gorrotxategi y al señor iriarte en aquella reunión

por lo tanto esa es lo que pasa es que ustedes hacen como pinito de oro en el circo price triple salto mortal señor lehendakari allí votan unas cosas aquí vienen a decir otra cosa de la ley de educación de la ley celaá y claro la señora pinito no tenía red
y tiene la red de sánchez y de iglesias que son sus socios y ese es el problema de ustedes del partido nacionalista vasco en esta tierra señor lehendakari muchas gracias eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz yo no sé si hacemos triple salto mortal

y no sé cuántas cosas sin red en cualquier caso esta ley es mejor que la anterior

lenguas currículo o modelo no creen ustedes problemas donde no los hay señor iturgaiz esto es lo que hizo la lomce la lomce que ustedes aprobaron

trató de limitar los contenidos del currículo propio quiso imponer las reválidas y sus contenidos para la obtención de un título pretendió condicionar el modelo educativo vasco

mire vamos a seguir trabajando para mejorar la equidad mejorar la calidad y mejorar la excelencia de la educación vasca con hechos este martes

en euskadi cuarenta millónes de euros para los centros concertados en euskadi que se suman a lo invertido en los centros públicos contamos con ciento cuarenta millónes para garantizar

invertimos de acuerdo con la comunidad educativa porque la educación necesita más que nunca consensos acuerdos y trabajo en común

es consciente de la diferencialidad con respecto al resto del estado

también la red concertada en euskadi la incidencia de la ley en euskadi o en el resto del estado la ley puede no satisfacer al cien por ciento pero estamos mejor

estamos centrados en lograr un amplio consenso en favor de la educación en euskadi nuestro compromiso es seguir mejorando día a día en el marco de nuestra propia competencia educativa

gracias presidenta buenos días señoras señores parlamentarios consejeros

hoy la pregunta va para usted señor erkoreka nuestra pregunta es qué actuaciones tiene previstas realizar desde el departamento de seguridad

ante la inseguridad que viven allí los vecinos a diario y que nos han trasladado eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea erantzuteko erkoreka jauna

su pregunta como bien sabe no es la primera iniciativa que se presenta en esta cámara y en esta legislatura en relación con el barrio bilbaíno de san francisco y a buen seguro tampoco será la última

y socialmente muy complejo en el que no son infrecuentes conductas y comportamientos ilícitos tanto desde el punto de vista administrativo como desde la perspectiva penal acabo de dar respuesta escrita a una solicitud de información documentada que usted misma ha formulado en la que

información en relación con la situación de seguridad de este barrio que yo creo que es muy

la ertzaintza tiene una presencia permanente en este barrio en estrecha coordinación

cada una de ellas en el ámbito de sus competencias aunque también se producen algunas intervenciones en el barrio de la policía nacional fundamentalmente relacionadas

la ertzaintza evidentemente va a continuar con la misma presencia centrada como viene siendo hasta ahora en la prevención y cuando esta no es suficiente en la persecución de los ilícitos que se pueden producir pero siempre con arreglo al principio de proporcionalidad y desde el más absoluto respeto a la dignidad y a los derechos y libertades de las personas eskerrik asko

la situación en el barrio de san francisco sabe usted que es insostenible usted lo sabe y sus compañeros en el congreso de los diputados también lo saben recuerdo a la perfección las palabras de aitor esteban diciendo que durante nuestra campaña electoral tuvimos problemas porque íbamos a unos barrios conflictivos

un barrio cuyos vecinos lo que piden una y otra vez es más seguridad pues necesitan implicación por parte de la administración

estamos en un punto en que los delincuentes campan a sus anchas los vecinos nos certifican que el pacto por la seguridad no ha servido absolutamente de nada y que la situación empeora día a día

auzokideak ha manifestado públicamente que los vecinos están desbordados

que viven atemorizados para salir de casa y cruzarse con determinados grupos muchos con hijos menores nos han trasladado que piensan mudarse a otro lugar porque este les produce inseguridad y además confirman que si aquí pasa algo nos salva nadie

entienden que de no solucionar esto convertirán este lugar en un gueto cuando vemos la prensa siempre aparece el barrio de un mismo modo navajazos peleas reyertas tiroteos san francisco y conflicto van de la mano pero no hacemos demasiado el último suceso destacable fue un ataque con espráis a la ertzaintza la semana pasada

completamente incapaz de enfrentarse con garantía a unos grupos que día a día van cogiendo confianza y luchan con más violencia contra nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado

fondos públicos se dedica a decir que el barrio en este barrio la policía abusa de poder y ejerce la

que no se puede seguir apoyando a organizaciones que atacan la labor de la ertzaintza

si como decía aitor esteban es un barrio complicado creemos que las medidas deben tomarse con urgencia nuestros ciudadanos no pueden vivir con miedo inseguridad y terror señor erkoreka esperamos que en su hoja de ruta esté solucionar estos altercados que se están produciendo a diario en este barrio al que muchos llaman ya

a la circunstancia de que su iniciativa no es la primera pero como seguro que tiene constancia de ello no todas se han producido en el mismo sentido que plantea usted

de la composición del parlamento hace posible que las perspectivas que se defienden desde los diferentes grupos parlamentarios sean no solamente distintas sino incluso antagónicas e incluso encontradas en relación con

en relación con las situaciones que se generan en el barrio yo he hecho referencia a la pluralidad a la complejidad social que entraña el barrio y hecho referencia y he reafirmado el compromiso de presencia de la ertzaintza allá en los términos en los que viene produciéndose hasta ahora en estrecha colaboración como no puede ser de otra manera con la policía local en cualquier caso

permítame hacerle un par de precisiones usted me pregunta

estas palabras en su exposición oral qué es lo que va a hacer el departamento de seguridad para garantizar la convivencia en el barrio de san francisco yo creo que no es un planteamiento

a ver por sí solo el departamento de seguridad no puede garantizar semejante objetivo el compromiso de garantizar la convivencia tiene que ser un compromiso plurinstitucional que afecta por supuesto a todos los niveles administrativos y que afecta de manera especial a los

extranjería garantía de ingresos inclusión dependencia etcétera etcétera y en segundo lugar la seguridad pública la defensa la protección de las personas y bienes y el orden ciudadano no pueden pasar por limitar

y de actuación de determinadas organizaciones y asociaciones legítimamente constituidas actúan y defienden sus puntos de vista con absoluta legitimidad y hemos podido comprobar que incluso en este parlamento

en la medida en que su actuación es lícita y se ajusta a los esquemas recogidos por el tratamiento jurídico evidentemente son acreedores del máximo respeto insisto va a continuar con su permanencia

y va a seguir actuando como decía sobre todo a través de la prevención y cuando no es posible siempre respetando el principio de proporcionalidad eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

ustedes hablan ahora de la crisis de la hostelería pero ocultan y le repito lo que le dije hace quince días también ocultan que en semana santa presionaron para cerrar toda la hostelería el comercio

propusieron el cierre total del país comenzando por la hostelería nos llegaron a acusar de primar

cuando se les preguntaba cómo sostener esa situación ofrecían una solución sencilla parar el tren de alta velocidad y subir los impuestos ustedes acaban de apoyar los presupuestos generales del estado

y sin subir los impuestos por supuesto los aprueban sin una sola medida de apoyo al sector de la hostelería que no tengamos en marcha aquí

en el anterior pleno de control y hemos venido insistiendo por estar vigentes también para el sector de la hostelería sino de las propias dirigidas a este sector

a las consecuencias e incidencia que el cierre preventivo está teniendo en el sector de la hostelería en sus más de

por supuesto que no por ello es por lo que hemos activado el programa de ayudas covid diecinueve para el sector con carácter urgente y procedimiento ágil aplicando los principios de eficacia

de contribuir al mantenimiento de la actividad y paliar las pérdidas económicas directas coadyuvando a la pervivencia física de los establecimientos una vez se supere

para la cuantificación de las ayudas ateniendo a la estructura empresarial según se disponga de hasta tres personas trabajadoras hasta diez

y desde más de diez hasta cincuenta personas trabajadoras ayer aprobamos en este parlamento vasco la resolución que contó con los votos favorables suficientes

en todo caso insisto la mejor ayuda comienza por nuestro compromiso individual cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias

señora presidenta lehendakari consejeros consejeras señora

señorías bien es una interpelación para seguir impulsando para seguir fomentando la economía social

de crisis donde puede tener un protagonismo especial y una fortaleza también especial en relación con muchas cuestiones con la generación de empleo la verdad es que el señor casanova ha sido un maestro en sacar carteles

algunos parlamentarios quiero decir que estamos en un momento importante

crisis por la pandemia donde unas fórmulas de economía como la economía social deben ser potenciadas y además están las bases en este parlamento y en esta sociedad

brevemente hace poco menos de un año la ley de cooperativas de euskadi fue aprobada

en este parlamento una ley importante con un importante respaldo y en este momento

aplicación de nueva aplicación y seguramente de desarrollo reglamentario del que también nos interesamos y bueno y de aplicación en múltiples aspectos porque es una ley larga una ley compleja y que afecta a muchas vertientes también en dos mil dieciocho

en este parlamento una comunicación del gobierno sobre economía social con una serie de resoluciones

muchas cosas cerca de sesenta resoluciones e interesantes de desarrollo de las políticas de fomento de la economía social en todas sus modalidades y en el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve por unanimidad aprobamos una enmienda de transacción a una moción consecuencia de interpelación sobre la redacción de un plan estratégico de la economía social bueno pues en eso

de cómo está esa situación porque hemos vivido momentos importantes también el país vasco bilbao fue escenario de un pueblo global de economía social en octubre del dos mil dieciocho

la importancia internacional de esta forma de economía por tanto internacional no es una palabra genérica es la importancia que le dan ámbitos tan importantes como la unión europea y su estrategia dos mil veinte su estrategia económica dos mil veinte la estrategia europea dos mil veinte como

o la propia naciones unidas donde adquiere la economía social un protagonismo especial bien en el país vasco hemos sido referencia

han sido importantes otras formas y otras fórmulas de economía social las sociedades laborales los centros especiales de empleo las empresas de inserción

las asociaciones con actividad económica que hay muchas las mutuas mutualidades las cofradías de pescadores las sociedades agrarias de transformación

en algunas de las comunicaciones que hemos debatido desde dos mil ocho en este parlamento las cajas de ahorro incluso han podido formar parte

y me refería en concreto también a un elemento importante

en naciones unidas en la sede donde se ha situado a la economía social como una de las prioridades de en las políticas de reconstrucción global para poder conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda dos mil treinta así que en ese sentido

tiempos de crisis tiempos de covid diecinueve pérdidas de empleo retroceso económico pero fórmulas que tenemos que utilizar y que el gobierno como

al que la señora mendia pertenece debe de utilizar y desarrollar además de por la necesidad en cumplimiento también de mandatos parlamentarios

de naciones unidas fue calificado un evento de alto nivel sobre financiación para el desarrollo de la era covid diecinueve en ese marco

fundamental se acordó fortalecer esas dentro de las medidas para asegurar una transición hacia un sistema más sostenible inclusivo un mundo resiliente con los derechos humanos y la igualdad de género en el centro son elementos importantes además que coexisten de una manera

formulaciones empresariales y que en ese sentido tenemos que ser capaces en una sociedad

para esas fórmulas diversificadas de empresa donde la economía social tenga un peso especial y vuelvo a decir el peso y la perspectiva que le dan

valoración global en crisis pero de cara a los objetivos dos mil treinta recordemos

la economía social tiene también un factor protagonista bien por recordar el pleno del parlamento vasco en sesión celebrada el diecisiete de octubre del dos mil diecinueve aprobó por unanimidad una moción y la moción decía tres cosas decía que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que a partir de la aprobación de esa iniciativa inicie los trabajos dirigidos

implementando los recursos económicos necesarios para su desarrollo todo ello para el impulso de la economía social en euskadi un elemento importante ese plan estratégico en relación con la economía social

se elaborase con la participación directa y activa de todos los agentes de la economía social de modo que responda a las demandas y necesidades de ese sector de la economía social todos conocemos a buena parte del sector su fortaleza su capacidad de asociación su impulso su preparación incluso

aparte de la práctica hay una universidad es decir hay elementos y

pública vasca tienen referencias y tienen ámbitos de estudio de la economía social y del fenómeno cooperativo desde luego que es comparable

del consejo superior de cooperativas o sea que

por eso mismo que en ese punto segundo pues ha hablado de los agentes que son muchos

el tercero era una referencia al informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas adoptadas a tal fin

estuvo ahí propiciaremos desde este grupo

en cualquier caso a la vista de estas cuestiones y por no extenderme más sí que me gustaría saber en el marco de esa capacidad de actuación del gobierno y de esos compromisos adquiridos

tiene previsto llevar a cabo el gobierno en relación con el proceso de elaboración del plan estratégico
de economía social que vuelvo a decir es algo importante para la generación de empleo y para la actividad económica muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

legebiltzar honetara itzuliko gara gizarte ekonomiako plan estrategikoa aurkezteko así que está muy claro el compromiso del gobierno también con ustedes

y con quienes contamos en el futuro para poder desarrollarla es una de las cuestiones que tendremos en la agenda que hablaremos con todos ustedes con los grupos parlamentarios

anuncié porque esa ley de cooperativas que conseguimos aprobar no es solo un apoyo inequívoco a la economía social es una actitud una forma de hacer política

es como creo que hay que hacer las cosas que se aprobara sin votos en contra demuestra que el departamento supo ver una necesidad y supo liderar un amplio consenso para ofrecer

que todos los grupos supieron ver que la economía social es una de las fortalezas que tenemos en euskadi que el movimiento cooperativo de trabajo asociado es puntero en europa y que queremos que siga siendo

seguimos trabajando con medidas concretas para que la crisis no las debilite

ante este parlamento pero es que esta apuesta inequívoca por la economía social está entre nuestras prioridades es el sexto de los ciento cincuenta compromisos que adquirimos con la ciudadanía para esta legislatura a través del programa de gobierno aparece expresamente del papel de la economía social con cuatro iniciativas expresas desarrollar la ley de cooperativas de euskadi apoyar el desarrollo de las empresas de economía social facilitando actuaciones dirigidas a reforzar su dimensión incorporar nuevas personas socias

apoyar la mejora de la gestión y planificación empresarial la formación y el fomento del buen gobierno y la responsabilidad social corporativa en las empresas de economía social

los proyectos de innovación tanto tecnológica como no tecnológica en las empresas de economía social en colaboración por supuesto con las asociaciones y agrupaciones del sector

como se puede imaginar no ha estado vacío de acciones hemos estado cumpliendo lo que prevé la ley y como le indicaba ultimando el estudio completo de la economía social

social que anualmente se diseñan y se publican ocho en total y hemos concluido la ejecución de las ayudas del año anterior en esto como en todo lo demás

sanitarias y económicas de la historia reciente y ahí también el departamento a través de la dirección de economía social ha estado muy pegado a las necesidades del sector la primera reacción de choque ha sido una línea específica de ayudas

la reestructuración de las líneas de apoyo ya existentes una reestructuración que ha supuesto incluso un aumento significativo del presupuesto en las de emprendimiento y asistencia técnica las ayudas de incorporación o estructura

porque son las que soportan finalidades esenciales como el incremento de la base societaria de las empresas de economía social la consolidación de sus estructuras o la formación específica además por supuesto del mantenimiento del observatorio de la economía social y las de intercooperación responsabilidad social empresarial y participación han disminuido en su cuantía la primera por su reducida demanda comprobada estos años y las otras dos por tratarse de actividades a desarrollar a más largo plazo la urgencia

y la prioridad ha sido atender sus consecuencias en la economía social por tanto han sido tres las líneas de apoyo específico a las empresas afectadas por el covid línea de emprender en economía social dos mil veinte que es una ayuda financiera para la consolidación de recursos propios destinado a fondos propios a reservas

euros para micro y mini empresas cooperativas y sociedades laborales creadas a partir del año dos mil quince por tanto

y que no estaban suficientemente consolidadas la segunda la línea de asistencia técnica en economía social es una ayuda de activación o continuidad empresarial para recuperar competitividad y mercado también para micro y mini empresas cooperativas y sociedades laborales el total destinado a este apoyo ha sido de ochocientos mil euros de los que quinientos cincuenta mil son

para micro y mini empresas cooperativas y sociedades laborales de hasta diez trabajadores aquí

nos hemos centrado en esas empresas especialmente débiles en su estructura económico financiera muchas de ellas como le decía de reciente creación y gracias a este apoyo han podido cumplir con sus obligaciones de cotización a la seguridad social principalmente pero también de renta del alquiler

por tanto además de trabajar en esto en lo urgente también hemos continuado trabajando en lo importante como es la elaboración de este plan

del plan estratégico son las siguientes se han ido elaborando los borradores de los diferentes pliegos tanto de cláusulas administrativas generales como las particulares y el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de asistencia técnica para la elaboración seguimiento y evaluación de un plan estratégico

social porque la evaluación y el seguimiento son herramientas de planificación fundamentales para la legislatura en materia de economía social y porque se trata de una actuación interdepartamental con distintas implicaciones presupuestarias

un mejor y mayor seguimiento dichos documentos están siendo analizados por los servicios jurídicos del departamento y una vez validados y habilitado el crédito presupuestario correspondiente para su financiación se formalizará el correspondiente concurso de pública concurrencia para su contratación así que señor barrio se lo he dicho desde el principio

en este gobierno por muchas cosas pero también por este compromiso nítido con la economía social que tiene el gobierno vasco así que muchas gracias

gracias presidenta gracias señora

conozco efectivamente el desarrollo de los planes del el gobierno en relación con el fomento y el impulso y el apoyo de la economía social me preocupo por ellos solo

decretos u órdenes de apoyo o de subvenciones y lógicamente

presupuestaria importantes inyecciones económicas o sea que en ese sentido yo creo hay que seguir funcionando en esas claves porque hay que definir yo creo que ya de una manera inmediata o

la nueva estrategia y hay que hacerlo de una manera además acertada y efectiva porque en economía social se medirá sobre todo en creación de empleo pero también se medirá en factores cualitativos en empleo de calidad porque hay que verlo

como ha sido hasta ahora en fórmulas de creación de nuevas empresas en fórmulas de creación de nuevas empresas algo muy importante porque hay que dinamizar nuevos emprendedores nuevas fórmulas de empresa y eso tiene un cauce muy importante a través de la economía social el estímulo a las fórmulas

dicho antes el desarrollo de zonas rurales en relación con estas cuestiones esas empresas agrarias de transformación esas cooperativas agrícolas es decir son elementos muy importantes que se están desarrollando

un impulso mayor una mayor estrategia sin duda además en épocas de crisis y muchos nichos de trabajo asociado que

dentro de poco alguna iniciativa de algún grupo parlamentario para hablar

en relación con los cuidados o con los nuevos emprendedores o con los jóvenes que quieren impulsar nuevas fórmulas de empresa o de participación societaria o sea que hay claves en plan de beneficio

sin ninguna duda por eso hay que actuar es decir y hay planes y hay referencias importantes en el mundo incluso en españa de planes estratégicos

el aprobado en la región de murcia además con una cuantificación económica pero con una serie

económicos y de desarrollo empresarial muy importantes vuelvo a decir con una importante además

por eso son refuerzos muy importantes esas líneas de actuación y esos apoyos económicos en definitiva nosotros sí que queremos impulsar esa acción del gobierno en relación con la económica social y con el plan estratégico

intervención me concretase algo más porque es decir ese mandato parlamentario

hace algo más de un año efectivamente hemos tenido la transición de gobierno y hemos tenido la crisis

actuaciones públicas pero en cualquier caso estamos hablando de un primer paso administrativo porque

y de pliegos es decir sí me gustaría saber cuál es el compromiso del departamento en relación

tratarlo nos gustaría hablarlo en el parlamento en la comisión de trabajo y empleo como hemos hecho

en el propio dos mil dieciocho con comunicaciones del gobierno importantes de referencia para la economía social y además que han impulsado más es decir cuestiones que tienen que ver en muchos ámbitos

por eso mismo sí que me gustaría saber esas características vuelvo a decir para recordar es decir la economía social no es algo

en alguna materia colateral de alguna asignatura de economía y que luego se

emprendedores pues la practiquen no es algo más es una filosofía empresarial es una filosofía económica

que tiene capacidad de emprendimiento así están tantas

informes antes nos hemos referido a la estrategia europa dos mil veinte

reiterados en relación con esta fórmula de economía resoluciones del parlamento europeo a muchas estrategias y a muchas claves de europa y del mundo en relación con algo tan importante como la economía social así que me gustaría

esa actuación del gobierno eskerrik asko barrio jauna mendia andrea zurea da

señor barrio evidentemente el primer paso que tiene que dar todo gobierno cuando tiene que elaborar un plan estratégico es

esos primeros pasos que usted califica de administrativos pero que son imprescindibles para conseguir el objetivo que creo que comparte toda esta cámara que es tener un buen plan estratégico que sobre todo al tratarse de un plan estratégico de economía social

evidentemente necesitamos también hacer un trabajo mucho más intenso y colaborativo dentro del seno del propio gobierno y tenemos que establecer

evidentemente todos los planes estratégicos que elaboramos en el gobierno en esta legislatura tendrán que estar alineados sobre la base de la primera estrategia aprobada por este gobierno a las pocas semanas de tomar posesión que es la estrategia

alineados también por supuesto con las líneas estratégicas que marque el gobierno de españa y que nos vengan marcadas desde la unión europea

humano y sostenible que pretende sobre todo ser consensuado necesitamos evidentemente que sea participativo ese plan estratégico sobre todo con el sector si queremos un plan estratégico será para consolidar más si cabe el sector de la economía social en euskadi y necesitamos porque los planes estratégicos o los planes si queremos que sea una herramienta realmente valiosa

al gobierno y al sector al que va dirigido tiene que ser una herramienta viva por lo tanto tiene que ser un instrumento dinámico para que pueda responder exactamente

cambiantes por lo tanto queremos que sea el mejor plan posible y con un grado de colaboración público privada importante

con usted tenemos el modelo de la economía social es un modelo que sirve de ejemplo en estos tiempos tan difíciles porque es un modelo comprometido de arraigo con el territorio con el empleo de calidad comprometido con el empleo de calidad con los salarios dignos a los modelos de deslocalización que en ocasiones sufrimos este es un valor añadido que reconocemos a la economía social y que queremos seguir poniendo en valor por lo tanto el gobierno está comprometido en elaborar este plan estamos ya en marcha

como no puede ser de otra manera a compartirlo con todos ustedes para dar cuenta de ese plan para recibir sus aportaciones pero como vuelvo a decirle

no solo sobre el tema que ocupa de esta interpelación que es la economía social sino sobre otras áreas

ha puesto de manifiesto una realidad muy reveladora en relación a lanbide el servicio vasco de empleo han constatado el fracaso

en lo que es la gestión de las ayudas sociales y en lo que es la empleabilidad de las personas que están desocupadas

es necesario que lanbide funcione de forma efectiva y que se pongan en marcha todas aquellas medidas que hagan posible que lanbide cumpla los objetivos que tiene encomendados y sobre todo como decía en un escenario tan complicado lo que no puede suceder

por ejemplo a la hora de gestionar unas ayudas concretas como sucedió con las ayudas a los autónomos pues lanbide no funcione de forma adecuada en ese sentido es necesario integral de lanbide servicio vasco de empleo también para que cumpla los objetivos en relación a la intermediación la formación y la orientación tanto de las empresas como de las personas que están en desocupadas

que lanbide no funciona adecuadamente y que no cumple los fines que tiene encomendados nos decía que eran plenamente conscientes de la reducida capacidad de intermediación que ha tenido lanbide en su despliegue

gran parte de una tarea pensada en la ley principalmente para otras cosas que lo que tenemos que hacer es conseguir que lanbide vuelva a ser el organismo que nació para intermediar para encontrar empleo

desde la coalición partido popular ciudadanos qué criterio va a seguir su departamento y usted desde la responsabilidad que ostenta para la consecución

para subsanar las deficiencias que actualmente presenta este organismo eskerrik asko garrido andrea erantzuteko mendia andrea

sus manifestaciones señora consejera ponen de manifiesto claramente la realidad de lanbide es decir no lo dice en este caso esta parlamentaria ni este grupo sino que usted reconoce que lanbide no está a la altura

a mí preocupa que usted en su respuesta me haya señalado que están analizando o que están viendo que no funciona mire cuando

en este ámbito en relación al departamento de empleo y políticas sociales la pasada legislatura era tanto la reforma de la renta de garantía de ingresos como la reforma de lanbide

creo sinceramente señora consejera que ese análisis tenía que ya estar realizado

claramente dónde están los problemas en lanbide y que ya tenían

encima de la mesa las soluciones por eso desde el grupo popular y ciudadanos le instamos a que de forma inmediata se pongan las pilas se pongan en marcha y realicen

para subsanar las deficiencias actualmente existentes ponerlo al servicio de la empleabilidad y desde luego

que los vascos que en este momento no tienen una oportunidad de trabajo la tengan a la mayor brevedad posible eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea mendia andrea

señora garrido las pilas este gobierno las tiene puestas y las ha tenido puestas

nosotros también sabemos hacer diagnósticos no todo está

y como le digo nosotros hemos empezado ya a trabajar desde cada oficina escuchando a los que están atendiendo el servicio público de empleo

en cada oficina donde queremos específicamente que se empiecen a notar los cambios y entre quienes acuden a demandar un empleo y entre quienes necesitan también demandar alguien a quien contratar en definitiva entre los trabajadores que buscan un empleo y entre las empresas que necesitan buscar perfiles concretos

un congreso de empleo en el que participan todo tipo de agentes a quienes hemos pedido que nos aporten y una de las mesas redondas se dedica precisamente a estos cambios necesarios para lanbide

primero escuchar y luego actuar pero ya anuncié que los cambios empezarán a sentirse desde el mismo año dos mil veintiuno tendremos mucho tiempo de hablar

sabemos lo que tenemos que hacer orientar y activar con planes lo más personalizados posibles pegados a las necesidades de las empresas pero además necesitamos tener una mirada muy especial a los mayores de cuarenta y cinco años a los jóvenes y a las mujeres que todavía las paganas de las crisis algunas porque no han conseguido engancharse al mercado laboral otras porque han salido expulsadas por la pandemia porque una vez más han tenido que

y tenemos que trabajar con ellas para que no renuncien a tener un proyecto si conseguimos todo eso corregiremos lo demás la tasa de intermediación es verdad le reconozco es muy baja y la ambición de este gobierno es mejorarla porque esa tiene que ser la finalidad pero yo quiero hacer un reconocimiento a los trabajadores del servicio público de empleo vasco por todas las horas y el trabajo desempeñado

no solo a las necesidades de las ayudas del covid sino también a todos los perceptores de las ayudas que se tramitan a través de lanbide su dedicación es total pero es verdad que tenemos que mirar al futuro es nuestra obligación y tenemos que mejorar es el reto que tenemos en el gobierno y para ello también una de las herramientas fundamentales serán las modificaciones legales que este departamento tiene en su horizonte legislativo
en esta legislatura muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

grafikaren momentu honetan el momento álgido de la producción

lan bat egin zuten eta esan zuten el único yacimiento de gas en españa

helburua bat no es un objetivo en sí mismo el gas el gas es una energía de transición y cuando hablamos de transición lo decía el lehendakari

ir hacia las energías renovables por supuesto pero tenemos que hacer esa transición estamos en el año dos mil veinte y en el año dos mil cincuenta si queremos llegar a un cien por ciento de energías renovables pues evidentemente tenemos que hacer ese camino y el gas

que es una energía de transición hacia ese camino pero vamos a los datos qué datos hemos obtenido qué beneficios hemos obtenido en euskadi respecto del gas

estrategia que se puso en marcha en los años ochenta y le voy a dar algunos datos en su momento pusimos en marcha la construcción de la red de gas en la que se invirtió por parte del gobierno vasco algo más de ochenta y cuatro millónes de euros y actualmente el eve mantiene un diez por ciento de enagás transporte del norte con lo cual seguimos haciendo esa apuesta

para el eve también un coste y en estos momentos tenemos una participación que asciende

qué retornos hemos obtenido del gas en euskadi pues hemos obtenido para el gobierno vasco cercano a los ochocientos cuatro millónes de euros desde dos mil cuatro que se han invertido en todo tipo de políticas en todo tipo de políticas por tanto la inversión realizada por euskadi en gas ha sido no solamente rentable económicamente sino rentable desde el punto de vista social y desde el punto de vista

utilizar esa energía como transición vamos al plan de negocio del proyecto viura que como usted bien sabe aunque no lo ha dicho

zerbait handiagoa da si analizamos la rentabilidad económica de shesa desde luego tenemos que decir que cuando se descubrió esta posibilidad este yacimiento

fue el más importante hallazgo del estado en los últimos veinticinco años en el dos mil doce se solicitó la concesión de explotación pero no fue hasta julio de dos mil diecisiete cuando tras una dilatada tramitación administrativa se logró la concesión el plan de desarrollo por tanto está en curso en este momento está en curso con un solo pozo productor y

es más complejo obtener esos resultados beneficiosos

se consigue del retorno de las inversiones que se han realizado por tanto si vamos a datos también como reflejan las cuentas anuales y usted las tiene

y en el dos mil diecinueve cinco coma cuatro millónes de euros es evidente que todavía queda inversión pendiente por amortizar pero no debemos confundir

se lleva en diferentes años como usted bien conoce también con las pérdidas que puede tener una empresa por tanto hay que conseguir analizar ese tiempo más prolongado y lo que hay que hacer además de todo

se explote de forma completa y en eso estamos en este momento quedan inversiones pendientes

y quedan inversiones pendientes de amortización que ascienden alrededor de trece coma seis millónes de euros

no es un año típico es un año complejo por la situación de pandemia que hemos vivido que también afecta a la situación vamos más allá y vamos a hablar de gas de kilómetro cero frente a gas importado porque creo que es relevante también en este debate si analizamos un estudio realizado por shesa en el año dos mil diecinueve con una consultora utilizando estándares iso catorce mil sesenta y siete catorce mil cuarenta

se ha calculado que las emisiones que se evitarían si todo el gas consumido por euskadi se produjera localmente ascienden a

una emisión de uno coma tres millónes de toneladas de ce o dos al año menos si es local que si es internacional esto equivale a

necesitaríamos quinientos dieciocho aerogeneradores de tamaño medio y necesitaríamos dos millónes y medio de árboles adultos

todo lo que es la perforación producción tratamiento y transporte del consumo de euskadi realizado con gas importado

lo que conseguiríamos es evitar un setenta por ciento de las emisiones de ce o dos con gas local

por tanto creo que producirlo localmente desde luego además de ser una energía de transición contribuye eficazmente a objetivos de descarbonización si no queremos

y admitimos que preferimos que sea un gas importado que venga de entornos se produce sin control público con menores exigencias en cuanto a condiciones laborales o ambientales incluso producido quizás con esa técnica

nosotros preferimos desde luego hacer una aportación a la reducción de emisiones de ce o dos con un gas explotado de forma local que explotado y después teniendo que venir de

en este momento si analizamos el gas del año diecinueve y del año veinte el gas que se ha consumido en euskadi ha venido principalmente de pozos de nigeria y de trinidad tobago cómo saber qué tipo de gas consumimos

insisto porque no es un objetivo en sí mismo el gas es una energía de transición y vamos a continuar utilizándola pero no de manera única

llegar a utilizar renovables junto con esa eficiencia energética de la que le hablaba y por eso también aprobamos la ley de sostenibilidad energética para conseguir aumentar esa eficiencia

una apuesta decidida por proyectos energéticos renovables en los sectores solar y eólico en primera instancia porque son los que más producen los más eficientes

sortzen den energia pero no es suficiente y después de un parón de muchos años alrededor de quince años

la más eficiente de todas las renovables también sea una realidad en euskadi y queremos poder iniciar la construcción de parques eólicos en euskadi en el dos mil veintidós para ello también hemos empezado con todas las tramitaciones administrativas en cuatro lugares diferentes queremos conseguir

esos trescientos megavatios en el año dos mil veinticinco provenientes de energías renovables pero para ello necesitamos poner en marcha nuevos proyectos pero además a través del ente vasco de la energía se están apoyando proyectos de renovables sea solar térmica geotérmica geotermia o biomasa a menor escala

empresas pequeñas administraciones y particulares y los resultados están permitiendo dar un gran impulso también al autoconsumo autoconsumo energético y térmico de tal manera que consigamos también democratizar ese tipo de autorización estamos en proyectos por tanto a gran escala y a pequeña escala

porque este año dos mil veinte se han puesto a disposición seis millónes de euros en ayudas para instalaciones de autoconsumo y a la fecha en este momento

de dos coma cinco millónes de euros y doce megawatios es decir todavía tenemos recursos para aumentar mucho estas ayudas y estos proyectos de autoconsumo

beste hirurogeita hamar kaleratze gauzatu dira las empresas aeronáuticas mencionadas han destruido cuatrocientos veintisiete empleos en estas semanas

porque el impacto en las pymes es más difícil de evaluar aunque sin duda también será importante

nos encontramos ante la desaparición de más del diez por ciento del empleo del sector aeronáutico vasco en las últimas semanas el diez por ciento del empleo de un sector

actuaciones a corto plazo en primer lugar para garantizar la supervivencia de este tipo de empresas del sector aeronáutico pero no solo del sector aeronáutico de tal manera que utilicemos todos los recursos a nuestra disposición para que si se tienen que producir algún tipo de ajustes se realicen de la forma menos traumática posible es decir podamos trabajar de la mano con todos y cada uno de los agentes para conseguir que a través de medidas de flexibilización general generación de bolsas de horas

de todo tipo de mecanismos se pueda garantizar esa supervivencia junto con herramientas excepcionales además

y flexibilizadas esas herramientas bideratu covid diecinueve que también se van a

del próximo año y actuaciones a medio y largo plazo dirigidas precisamente a esas actuaciones que usted decía si se van a producir

de empresas evidentemente el gobierno vasco tiene herramientas suficientes a través de sus fondos tanto público privados como públicos únicamente para tomar participación y alentar esas fusiones y en el caso del fondo

que va a poner en marcha el gobierno del estado estamos en conversaciones con el gobierno del estado para que también podamos participar y aportar financiación a ese fondo no es la única actuación no podemos olvidar la de largo larguísimo plazo podemos decir

nuevos combustibles y nuevos motores también tiene que ser parte de nuestra actuación y así está contemplado y acordado con el gobierno del estado eskerrik asko

cuánto dinero se puede ahorrar en costes laborales en un año cinco millónes ocho millónes una empresa que factura setecientos millónes de euros al año

yo creo que se pueden buscar otras vías sobre todo porque todos sabemos que el sector está en una crisis coyuntural que quizás dure

o aernnova de siete millónes tiene que durar algo más de lo que dura la entrevista en el medio de comunicación

tienen que ser asertivos y tienen que ser exigentes con esas empresas que han recibido fondos que tienen el riñón forrado porque han ganado cientos de millónes en los próximos años y que

exigentes en el sentido de plantear de que estas ayudas presentes pasadas y futuras tienen que ir acompañadas
por una corresponsabilidad de las empresas en defensa del empleo cuando vengan mal dadas eskerrik asko casanova jauna

pero también mirada al futuro y para mirar al futuro hay que hacer inversiones

a través de esa iniciativa creo que tenemos que continuar en esa senda también por parte del gobierno vasco ser exigente sí pero atender a ese corto

el cierre de la hostelería decretado a primeros de este mes ha sido lo más parecido a la entrada de un elefante en una cacharrería se ha cerrado la hostelería se les dice a los hosteleros que pierden su modo de vida y les dicen también que en fin que ya iremos viendo lo peor no es el cierre sí que es trágico

sino la absoluta falta de seguridad jurídica en la que se deja a estos empresarios

genera empleo paga sus impuestos a pesar de las insinuaciones de su gobierno y además las administraciones las utilizan como recaudadores

sin anunciar el marco jurídico en el que se va a desarrollar esa situación con posterioridad qué ha sucedido en euskadi qué han conseguido con sus acciones inacciones y declaraciones en primer lugar lo que se ha conseguido es la criminalización de la hostelería parece que los hosteleros son los responsables principales de los contagios hay estudios que demuestran justo lo contrario les cito solamente dos hay uno de la asociación de mutuas de accidentes de trabajo que

con la exposición en el lugar de trabajo en este caso bares y restaurantes y hay otro que lo reduce

que por lo demás va en consonancia con lo que se ha detectado en otros países inglaterra holanda donde los locales de hostelería

y el tres coma ocho en holanda en españa según este estudio aproximadamente el tres y medio en todo caso en segundo lugar

pues mire se ha generado incertidumbre no hay un plan de actuación en esta materia por parte de su gobierno algo tan sencillo como decirle a los hosteleros a qué atenerse a qué atenerse

con qué metodologías además una descoordinación entre administraciones problemas de tramitaciones brechas le voy a poner tres brevísimos ejemplos el euskadi

entre pequeños comerciantes y también hosteleros para que en ese tipo

el equivalente a los bonos que gastaran sus clientes el período aproximado de una semana pues bien ha habido comerciantes que han tenido que esperar hasta tres semanas para poder cobrar y en muchos casos incluso adeudándoles más de dos mil euros que es una cantidad muy importante para este tipo de comercio eso sí para inscribirse en el programa

al día y perfectamente con las cuentas en orden en segundo lugar en el ayuntamiento de bilbao pues también hay un bono que solamente se puede adquirir en unos momentos determinados a través de una conexión a internet en un periodo muy determinado

que no todas las personas que podrían tener derecho a acceder a él pues pudieran disfrutarlo y la diputación foral de bizkaia los hosteleros que hacen de recaudadores recaudan el iva incluso recaudan el iva

y además a los pequeños empresarios no se les permite fraccionar pagos por cantidades mensuales de menos de ciento cincuenta euros que puede parecer una cantidad

para estos pequeños empresarios que incluyen no solamente a la hostelería sino también al pequeño comercio como ve usted señor azpiazu la situación es más que crítica y como esto va para largo y ahora

de apoyo a la hostelería tiene previsto incluir en el proyecto de presupuestos de dos mil veintiuno eskerrik asko gordillo jauna

eusteko comparto menos el hecho de que la justificación

y muy alejadas en todo caso de los cálculos realizados por el propio sector en mi opinión esta afirmación es cuanto menos inexacta ya que más allá de los anuncios el gobierno vasco ha adoptado las necesarias actuaciones que las administraciones públicas deben adoptar para minimizar los efectos económicos

el sector de la hostelería no ha sido ajeno a estas iniciativas económicas y por lo acontecido este mismo mes por ejemplificar el último de los programas aprobados y no repetir ninguno de los anteriores que han sido bastantes nada puede reprocharse al gobierno en relación a la tardanza

y le diría más del modo en que su grupo parlamentario las ha reivindicado en más de una ocasión con ayudas directas directísimas por estar en una determinada situación

a cuentagotas son decisiones trascendentes que el gobierno ha entendido proporcionales transparentes y que por lo que se ve en la ejecución que las solitudes van teniendo van a suponer una ayuda importante para los sectores

dirigido pasando directamente a abordar la pregunta lo que a día de hoy puedo decirle es que el presupuesto para el ejercido dos mil veintiuno es un presupuesto ordinario con medidas ordinarias para las políticas públicas que en el caso concreto del que estamos hablando afecta en este sector de actividad como cualquier otro presupuesto

prosigue e incorpora las ayudas extraordinarias que a lo largo del ejercicio dos mil veinte han supuesto y supondrán compromisos de gasto plurianual

y que en el caso de que sean necesarias buscará y encontrará financiación a través de los mecanismos presupuestarios habituales para cualesquiera medidas extraordinarias que sean necesarias

es que el programa de avales en el que ha habido reservas concretas para este sector

estará presupuestado y figurará en el texto articulado del proyecto de ley en iguales términos que este año esperemos que el sector de la hostelería y por extensión

a esos prestamos en buenas condiciones eskerrik asko azpiazu jauna gordillo jauna hamabost

señor azpiazu como usted lo pinta parece que la situación es ideal y nada más alejado de la realidad hable con los hosteleros a ver qué opinan en todo caso simplemente le reitero desde aquí que cuenta con nuestra mano tendida para que los presupuestos dos mil veintiuno cuenten con partidas suficientes para que cuando la situación lo permita

a los presupuestos del gobierno que seguramente además como van a ser muy buenos no va a tener casi usted otra oportunidad y otro remedio que hacerlo pero

de las medidas pero como entenderá ni siquiera el consejo de gobierno es conocedor aún del proyecto de presupuestos que acabará estudiando el próximo día quince de diciembre

parlamentaria que usted mismo preside información exhaustiva

en nombre del gobierno las medidas presupuestarias por las que usted pregunta hoy y le daremos supongo la satisfacción que usted hoy nos demanda eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta hablemos de innovación señor consejero y antes de nada debo pedirle disculpas porque

a la hora de dirigir esta pregunta si debía ser usted el destinatario o debía ser la consejera

yo diría que no está solamente horizontalizado sino que está difuso pero en cualquier caso

y que también el gobierno vasco debería de darle más importancia de la que le da actualmente porque la innovación es un buen indicador de la salud de euskadi

interesante a pesar de que agencias como innobasque por ejemplo cuando habla de la salud de la innovación pues no lo tenga en cuenta utiliza otros indicadores que le convengan más

y al respecto mi pregunta se basa en un puro dato

sin ningún tipo de interpretaciones según datos de eustat

la situación de euskadi es ligeramente inferior a la de la unión europea pero uno de los datos que se desprenden de dicho informe

la solicitud de patentes en euskadi se ha visto reducida en un nada despreciable cuarenta coma diecinueve por ciento y la pregunta es sencilla

la solicitud de patentes es uno de los tres indicadores que conforman la evolución de activos intelectuales del panel europeo de indicadores de innovación european innovation

un panel que se estructura en cuatro bloques principales con diez dimensiones para un total de

a partir de los cuales se calcula un índice compuesto que refleja el peso de las distintas dimensiones el objetivo principal de este panel es precisamente realizar

del rendimiento en innovación de los estados miembros de la unión europea y conocer las fortalezas y debilidades de los sistemas de investigación e innovación siendo la solicitud de patentes

uno de estos veintisiete indicadores pero uno el rendimiento en investigación e innovación debe valorarse en el conjunto de los indicadores de dicho panel en ese sentido de acuerdo con el informe publicado por el eustat el pasado veintiocho de octubre del dos mil veinte

euskadi ha afianzado su posición entre los países europeos con alta innovación de acuerdo con el

por la dilución del indicador entre otros muchos indicadores pero creo que estará el señor consejero de acuerdo conmigo en que no es un indicador más

bueno no nos queda más remedio creo yo que a la vista de al menos ese indicador sea uno más entre veintisiete o sea uno solo

y entiendo que no es un problema que le podamos achacar a usted señor consejero que acaba de llegar prácticamente hace poco al gobierno vasco pero sí que es verdad que esto refleja una vez más el mito este de la buena gestión que durante años el partido nacionalista vasco

qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo con la innovación en euskadi para que ejercicio tras ejercicio según el indicador de las patentes estemos suspendiendo de forma tan alarmante pues le voy a decir algo que sí que estamos haciendo y que en parte explica ese resultado

en un notable ejercicio de puertas giratorias ha nombrado recientemente

justamente su predecesora que ocupó el puesto de consejera de educación desde dos mil dieciséis y que es la responsable de estos resultados tan desastrosos

es decir se ha puesto como responsable de innovación a la persona bajo cuyo mandato

lo cual muestra la verdadera importancia que este gobierno otorga a la innovación

queríamos transmitirle dos mensajes primero creemos que hay que cuidar a los investigadores que son al final los que generan las patentes y segundo mensaje que tienen que tomarse en serio la innovación porque la innovación es el futuro
es el largo plazo y también es el corto plazo gracias eskerrik asko

el rigor es uno de los elementos yo creo que más importantes a la hora del debate y del análisis y como le he indicado en mi primera intervención

el valor de innovación en euskadi está en la media europea y al nivel de grupo de países con alta innovación como son bélgica alemania irlanda francia estonia y portugal le voy a

donde la columna azul es la media europea con cero coma cincuenta y uno y al lado está

y detrás de lo que son estonia portugal chipre se encuentra españa

es decir como les acabo de indicar en mi anterior intervención el dato de solicitudes de patentes no debe considerarse como un indicador aislado

referentes al impacto al impacto en los empleos o el impacto en las ventas o al impacto en la investigación atractivos

los sistemas de investigación atractivos euskadi destaca por encima de la media europea y ha evolucionado de forma significativa en los últimos años y ese es el dato objetivo por ejemplo en lo relativo al número de publicaciones científicas indexadas se ha duplicado la producción científica en una década o sea se ha duplicado incrementando igualmente

de forma que entre dos mil nueve y dos mil diecinueve euskadi ha aumentado en más del doble su producción científica tal y como tuve la oportunidad de trasladarles recientemente la presentación de las líneas generales para esta legislatura nuestra apuesta por la investigación e innovación

este gobierno tiene el firme propósito de aumentar en un seis por ciento de media anual las inversiones

dado que la investigación y el desarrollo científico y tecnológico son condición necesaria para la prosperidad económica muchas gracias eskerrik asko

gracias presidenta buenos días de nuevo consejera consejeros señorías

nos interesamos en esta interpelación por la utilización de todos los recursos disponibles para combatir el virus y nos interesamos e interpelamos sobre el papel de la farmacia comunitaria en este caso

el ministerio y en el seno del ministerio de sanidad y en el seno del consejo interterritorial

hizo una propuesta el pasado dieciocho de noviembre en relación con el papel

de las farmacias de la farmacia comunitaria la farmacia familiar en las actuaciones sobre covid

el señor illa abrió la puerta a que las farmacias participaran en actividades

mediante la aplicación de test rápidos esa puerta se abrió

a las comunidades autónomas que quieran implementar esta medida que presentaran un plan detallando la forma de hacerlo y bueno y eso fue lo que se anunció al final de la reunión del consejo interterritorial del pasado

labor de la red de farmacias no y bueno y ya señaló que para que esos establecimientos puedan participar en esos

de acuerdo con las necesidades con las capacitaciones qué tipos de test se iban a utilizar qué personal se iba a utilizar si iban a haber circuitos covid no covid en la red

cuestiones que están planteadas que están planteadas y que bueno

de lo que la farmacia comunitaria dice y

recurrir a estas colaboraciones con las oficinas de farmacia y en otros países ya

una práctica habitual hemos visto

interesante en la prensa vasca en un medio guipuzcoano un interesante reportaje sobre lo que

que se titulaba negativo en diez minutos y describía una interesante situación

la realización de los test de una oficina de farmacia capacitada

de irún a un paso en relación con algo que estaba muy bien organizado en francia en este caso en este caso en hendaya y en las farmacias comunitarias de

la unión europea que bruselas valida que las farmacias puedan hacer test de antígenos y muchas más cuestiones que podrían hacer

ese planteamiento estamos viendo que madrid y que cataluña ya están preparando los protocolos en relación con estas cuestiones

otros países y además hay una cuestión que es la fundamental en relación con esta circunstancia y que todos lo sabemos las farmacias

y perfectamente capacitadas para asumir esa responsabilidad de colaboración con la administración en algo que es importante que es el aprovechamiento integral de los recursos en la lucha contra la pandemia en la lucha contra el covid y las diferentes funciones y necesidades que se tienen

la disposición y la capacitación y la preparación están ahí ahora lo que tenemos que analizar y lo que queremos

es cuál es la actitud o cuál es el planteamiento en este caso de la administración del departamento de salud en relación con esa propuesta que ya está validada por la unión europea que ya se lleva a cabo en otros sitios y que goza de una disposición y una capacitación importante por quienes pueden sumarse a esa responsabilidad hay un documento muy interesante

donde se analiza una gran pregunta por qué realizar test rápidos de detección de coronavirus sars cov dos también en las oficinas

y además hay como diez respuestas o diez planteamientos ampliamente explicados lógicamente no se lo voy a hacer aquí porque llevaría mucho tiempo pero

porque en la actualidad es necesario detener la propagación del covid diecinueve explica por qué porque el sistema nacional de salud también

hay una posibilidad de esa colaboración que es ejemplar en otras cuestiones

pues porque el farmacéutico es un profesional sanitario universitario capacitado

actividades en este caso de estos test como también podría serlo

en el caso de que pueda ser necesario no hacerlo masivamente a la población ese es otro de los elementos por qué porque son establecimientos sanitarios que ya forman parte del sistema nacional de salud haciendo efectiva la prestación farmacéutica no hospitalaria a la población son las farmacias comunitarias unos establecimientos sanitarios privados de interés público sujetos a planificación sanitaria por las administraciones

porque más pues porque hay una demanda ciudadana creciente en relación con la posibilidad de encontrar estos ámbitos sanitarios y en el caso de la realización de test también porque la red

proximidad accesibilidad y cobertura del noventa y nueve coma nueve por ciento de la población elemento importantísimo porque la población confía

y eso es verdad lo dicen todas las encuestas como elemento de referencia porque muchas farmacias ya prestan servicios similares a la población hay que recordar que es habitual que los pacientes y usuarios acudan a la farmacia a realizarse pruebas de autocontrol de parámetros clínicos por dígitopunción como la glucemia el colesterol incluso de forma concertada con varias administraciones sanitarias autonómicas pruebas como las test

hay una preparación esencial en relación con este colectivo porque un gran número de farmacéuticos comunitarios y farmacias lo están demandando por colaborar en la gestión de la crisis sanitaria porque hay esa disposición activa porque hay esa preparación

y los recursos para hacerlo al más alto nivel y porque ya están en red además lo más importante también

con el sistema nacional de salud y pueden garantizar la trazabilidad de los resultados

hay una preparación hay una posibilidad hay cobertura hay disposición y en ese sentido para implementar

ámbitos de actuación en la lucha contra la pandemia de una manera esencial

podría serlo en la vacunación ya anunciada desde luego

por el ministerio y por el propio presidente del gobierno en relación

de actividad es decir para neutralizar los efectos de la pandemia o sea que en ese sentido encontramos un ámbito de colaboración por eso mismo habido abriendo las puertas no solamente el ministerio sino la propia

y esta necesidad viendo la disposición la capacidad la competencia las posibilidades de las farmacias en relación con la colaboración de la administración sanitaria

realidad en otros países también en relación con posibles cuestiones de colaboración en la vacunación pero bueno y estamos hablando más concretamente del test de detección

en la lucha contra la pandemia todo puede ser una actividad integral pues nos gustaría saber del gobierno cuáles son los propósitos en relación con la participación activa de las farmacias en la atención ciudadana por la pandemia covid diecinueve en este caso pues en la posibilidad de realizar las pruebas de detección del virus y en el futuro

haya que emplear muchos medios en muy poco tiempo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna sagardui andrea zurea da hitza

andrea legebiltzarkideok sailburua egun on señor barrio tengo que reconocerle que algunas de las afirmaciones que ha hecho durante su discurso me han sorprendido pero voy a tratar de

una relacionada con la participación de las farmacias en la realización de pruebas diagnósticas para la detección de covid y otra relacionada con su participación en el anunciado plan de vacunaciones pues bien con respecto a la primera cuestión

en su discurso que el ministerio ha abierto la puerta a que las farmacias participen en la realización de pruebas de detección covid yo matizaría mucho esa afirmación porque se trata de una manifestación realizada

de sanidad español en el seno de la comisión interterritorial del sistema de salud de la semana pasada dieciocho de noviembre a la que yo

en primer lugar fue que la unión europea desaconsejaba

y que desde europa se valida además la estrategia que se está realizando en conjunto en el estado español y a renglón seguido explicó que de la misma manera tampoco compartía

pero pero que si alguna comunidad autónoma pensaba hacerlo debería presentar un informe

muy detallado sobre cómo pensaban realizar un informe muy detallado de los protocolos

muy detallado de la gestión de las pruebas un informe muy detallado de la información generada que el ministerio estudiaría exhaustivamente

en la comisión interterritorial aún más le voy a decir yo la agencia española de medicamentos y productos sanitarios en su nota informativa de veinte noviembre respecto a la adopción de una recomendación por parte de la comisión europea para el uso de test rápidos de antígenos en la unión europea

capacitado para llevar a cabo la toma de muestras el ensayo la interpretación de los resultados y la comunicación posterior a las autoridades de salud para ello deben seguir estrictamente las instrucciones de uso del fabricante y realizarse durante los cinco días posteriores al inicio de los síntomas o siete después de la exposición a un caso confirmado de covid hemeretzi por tanto actualmente

no cumplen los requerimientos legales vigentes si a lo que usted se refiere es no ya a hacer los análisis clínicos

hay que entrar en otro tipo de consideraciones sobre espacios físicos necesarios formación específica de los profesionales equipos de protección individual y bioseguridad de todas las personas que conviven en dichos espacios

recoger una prueba de saliva que realizar la toma de una muestra de mucosa nasofaríngea

a día de hoy esa es una técnica del ámbito de la enfermería formar se puede formar a casi cualquier persona en la realización de casi

pero no es esa la cuestión estamos hablando de una técnica que han de realizar personas con la cualificación adecuada los locales es posible que haya muchas farmacias que tengan unas instalaciones que permitan la realización de las pruebas en condiciones de seguridad y confidencialidad pero seguramente

la información es crucial que la información de las personas sometidas a pruebas y sobre todo las que den resultado positivo a la presencia de covid llegue a tiempo y forma a los equipos de rastreo y seguimiento de la información

y finalmente la utilización de los test de antígenos la iniciativa sobre la participación de las farmacias en la detección del virus no parece venir vinculada a la realización de las pruebas pcr sino a las pruebas rápidas de detección de antígenos porque las primeras requieren un protocolo de envío de pruebas a laboratorio procesado y gestión de la información que osakidetza tiene perfectamente canalizada

aquellas que permiten obtener una respuesta en pocos minutos

la indicación inicial de las pruebas de antígenos es para personas que tienen síntomas compatibles con la covid

está resultando de gran utilidad en los servicios de urgencias y en la atención primaria para diferenciar rápidamente a personas que han desarrollo la enfermedad

con quienes han dado positivo y que a pesar de no tener síntomas tienen una gran carga vírica normalmente miembros de una misma unidad familiar este es el uso que le estamos dando en euskadi el que entendemos el más apropiado para el resto

las pruebas pcr son como tender sobre la población una red muy tupida de malla muy cerrada para detectar casos positivos lo hacemos bien sobre personas que han sido contacto de otras que han dado positivo o bien sobre municipios que tienen altas tasas de incidencia el resultado es identificar positivos y evitar con el confinamiento que contagien a otras personas

usándolos masivamente también se pueden detectar personas asintomáticas

todo lo que se detecte es importante pero hay que tener presente que hay positivos que no

en estos momentos tenemos una red de rastreadores y rastreadoras muy importante

que han llegado a facilitar la realización de más de

en un solo día en estos momentos no es necesario llegar a tales cifras por dos razones primero porque el número de positivos afortunadamente está siendo cada día menor y en consecuencia el número de contactos

también está disminuyendo y segundo porque desde la adopción por el labi de las medidas vigentes de contención de la actividad y la movilidad en euskadi el número de contactos estrechos de las personas que han dado positivo es también menor

para el departamento de salud las farmacias son un agente crucial en las políticas de promoción de la salud de la ciudadanía la colaboración con ellas es

y nuestra voluntad es seguir mejorando esa relación que ya es buena eso sin duda pero en el aspecto concreto por el que nos interpela son muchas las cuestiones a resolver antes de plantear la posible participación activa de las farmacias en la realización de pruebas de detección

gracias presidenta gracias consejera por sus palabras por sus explicaciones en relación con esta interpelación bueno hay una puerta abierta por lo que veo es decir hay muchas cuestiones que resolver

pero lo fundamental es que las farmacias y la sociedad española de farmacia familiar comunitaria sus asociados sus miembros los colegios profesionales están perfectamente

saben perfectamente que lo pueden hacer y saben perfectamente que esas cuestiones a resolver

cuando hacía referencia al plan detallado que tiene que presentar son las que tienen que resolver y están sobre eso por eso le he leído los diez puntos

por supuesto que se está o sea que en ese sentido se pueden resolver algunas cuestiones o sea que hay una puerta abierta también aquí como la hay en otros países

veo lo que los medios de comunicación trasladan a la sociedad yo no estaba

del consejo interterritorial ni he estado en sus reuniones pero yo

los medios de comunicación y las referencias que nos han llegado por eso mismo me tengo

lo que he leído en algún medio de comunicación especializado además o sea quiero decir que en relación con

se estaba hablando no y lo dijo en una rueda de prensa lo abrió y dice

absolutamente de acuerdo además en las cuestiones vuelvo a decir

qué personal se va a utilizar si va a haber circuitos covid no covid como en la red sanitaria cómo van a suministrar los datos a los servicios de salud pública o si el personal que lo va a realizar es conforme a las características que indica el fabricante es decir

en esas diez respuestas a preguntas los farmacéuticos ya son capaces de resolver y ya han hablado de eso usted decía también claro que se necesita una capacitación y una formación por supuesto

y los farmacéuticos ya lo tienen resuelto también porque en relación con lo que es

la pues la ley cuatro barra dos mil tres de profesiones sanitarias en relación con este tema ya a partir de ahí y cuáles son la responsabilidad entre ellas de los farmacéuticos ya

profesión ya se ha encargado desde el mes de mayo de realizar cursos de formación ad hoc para actualizar los conocimientos de los farmacéuticos comunitarios

esa información es la basada en los procedimientos científicos y en los procedimientos técnicos o sea que la farmacia

profesionales universitarios que desde luego este tema es conocedor y además intervienen en muchas otras cuestiones de detección y de análisis

por dónde actuar yo para finalizar yo quiero decir que además

la privacidad pues los farmacéuticos ya saben hacer otras pruebas ya saben que la privacidad va a estar asegurada

está bien claro que nunca ha habido un problema en nuestras farmacias en relación con la privacidad de estas pruebas así que eso también está garantizado y yo quiero decirle para finalizar que

situación por qué es necesario que la farmacia comunitaria se sume a los centros de salud en la detención del coronavirus bueno esas preguntas

de pacientes pueden ayudar a detectar las farmacias comunitarias que no son susceptibles de acudir a los centros de salud eso es muy importante también

ya se ha demostrado que sí que lo pueden hacer o sea son las farmacias comunitarias espacios seguros hay que garantizarlo hay medidas para hacerlo qué fiabilidad tienen este tipo de pruebas

para hacerlo cómo sería la coordinación con los centros de salud y de la red epidemiológica está bien claro que si alguien está bien coordinado y es colaborativo son los farmacéuticos y las farmacéuticas comunitarias la red pública y eso ha sido ejemplar además en los convenios y además aspectos tan importantes como cómo debería ser la financiación de este servicio son fáciles de resolver

que la puerta esté abierta sería la mejor noticia muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko sagardui andrea

usted es capaz de decir desde la información que usted tiene que será mucha y válida que se garantiza se garantiza se garantiza cuando el ministerio de sanidad no dice nada de eso y digo yo que es el competente en la materia que tiene que tener conocimiento y cuando está pidiendo

en lo que ha basado su intervención no está así de claro

respuesta a la segunda parte de su iniciativa a la de la participación de las farmacias en el anunciado plan de vacunación que ahora usted no ha hecho mención solo se ha referido a las pruebas diagnósticas

de salud para explicar la evolución de la pandemia en euskadi y para hablar de las medidas de todo tipo que se están aplicando en la lucha contra el virus

que existe un grupo de trabajo de expertos y expertas en vacunación provenientes de las diferentes comunidades autónomas que son las personas encargadas de definir cómo

la covid en el estado español una vez que la o las vacunas estén ya a disposición de los estados miembros de la unión europea que es la que ha centralizado las compras como dije entonces el plan de vacunación pasó directamente del grupo de expertos

sería objeto de mucha atención en el consejo interterritorial que celebramos ayer inmediatamente después anteayer perdón inmediatamente después de la comisión parlamentaria

en el que están trabajando el personal técnico que tiene asignada esta tarea pues bien no fue así

ni su tramitación ni su contenido y consecuentemente la participación de las farmacias en el proceso de vacunación ni en el proceso de toma de muestras ahora

vamos a celebrar las navidades en cualquier caso en estos momentos no sabemos el tipo de vacuna que llegará a primero

de qué características cuándo la harán qué requisitos de transporte almacenamiento y administración tendrán lo que sí sabemos y eso es seguro es que nos corresponderá a nosotros a osakidetza

y esto es algo en lo que tenemos experiencia hemos administrado más de quinientos mil vacunas de la gripe entre octubre y noviembre un cincuenta por ciento más que el año anterior

tenemos la logística el personal y la experiencia de manera que no creo que sea necesario recurrir a las farmacias para administrar la vacuna

y es que lo cierto es que entre dos mil once y dos mil dieciocho la oferta de residencias públicas y concertadas apenas ha variado se han creado muy pocas plazas lo oferta evidentemente no ha evolucionado a la par del proceso de envejecimiento progresivo de la sociedad y por lo tanto

considerablemente el desequilibrio entre la oferta pública y la demanda por parte de la ciudadanía los datos consejera son verdaderamente y absolutamente terroríficos de miedo en araba por ejemplo en dos mil once contaba la red pública y concertada con novecientos ochenta plazas

es decir solo se han abierto sesenta y uno plazas en siete años

más de lo mismo si bizkaia contaba con cinco mil cincuenta y tres plazas en dos mil once

nuevas en siete años en gipuzkoa la evolución no ha sido tan mala y sí que la red

que en dos mil once muchas de ellas cuando euskal herria bildu gobernó fueron abiertas

es decir la red pública de atención residencial se ha incrementado un

un cuatro coma cinco por ciento en siete años un cero coma seis por ciento anual en lugar de crear nuevas plazas

tal y como estaba previsto en el plan estratégico se ha apostado por las prestaciones económicas vinculadas al servicio eta zer dira prestazio hauek

eta plan estrategikoaren kontra una prestación económica con carácter provisional

birlibirloque se le ha dado un carácter permanente una clara apuesta por

la apertura de nuevas plazas en la red pública para dar cheques y derivar a las personas mayores a residencias privadas los datos como le decía no pueden ser más reveladores se ha pasado de repartir mil ciento cincuenta y siete cheques anuales

cheques anuales un incremento del ciento sesenta por ciento

la red pública la red pública incrementaba su número de plazas en un cuatro coma cinco por ciento el contraste es francamente impresionante como para avergonzarla consejera como para avergonzarla pero la situación en los centros o en la red pública de centros de día

negativa entre dos mil once y dos mil dieciocho la red pública de centros de día en araba y en bizkaia ha perdido doscientos diez plazas

es que incluso hay menos plazas de las que había en dos mil once todo lo anterior supone un enorme negocio para las empresas un enorme negocio más de doscientos diez millónes de euros desviados en solo nueve años y claro esto ha despertado el hambre y la avaricia de grandes grupos relacionados con fondos de inversión extranjeros especializados en gestión geriátrica cuya presencia

residencial vascas solo dos noticias del año pasado la primera de ellas un fondo de inversión compra cuatro residencias de mayores en bizkaia por más de cuarenta millónes de euros otra noticia también del año pasado

geriátricos irrumpen en álava y gestionan ya un tercio de las plazas privadas una prestación económica que decía que se había convertido por arte de birlibirloque por arte de birlibirloque

en la mitología moderna pirata caminar por el tablón

utilizado entre ellos consistía en forzar la víctima caminar sobre un tablón que se extendía desde un costado del barco

los paralelismos son más que evidentes las familias que acuden al sistema vasco de servicios sociales en busca atención y cuidado caminan sobre un estrecho tablón muchas veces se ha hecho insostenible en el hogar los difíciles equilibrios mantenidos hasta la fecha sostenidos más allá de lo razonable por la ética reaccionaria del cuidado se han roto en imposible equilibrio caminan sobre un estrecho tablón vosotros cuando llegan así

esto un cheque un cheque les dais un cheque los arrojáis al mar al mar del mercado un mar donde hemos visto cómo abundan los tiburones en matrix reloaded merovingio se dirigía así a trinity morfeo y les decía verán solo hay una constante una verdad universal es la única verdad causalidad

reacción causa y efecto consejera causa y efecto política extrema de privatización también tiene sus efectos sus graves efectos

en segundo lugar segunda condición para que este modelo funcione es abaratar el coste del servicio es decir la diferencia entre el cheque servicio y el coste del servicio

tal vez podría preguntarle a la directora de emakunde cómo se consigue abaratar el coste de un servicio donde el setenta por ciento del mismo

seguramente que me explica que solo se logra precarizando las condiciones laborales y salariales de miles de mujeres cuidadoras por ese motivo tienen a cuidadoras en álava con salarios

y con cargas de trabajo absolutamente brutales causa y efecto consejera causa y efecto

hablemos ahora de las pretensiones de su evaluación primer punto

dos leyes y un decreto pretende legalizar este proceder y para ello cuantifica estos cheques a efectos

segundo punto legitimar este uso tercer punto

dentro del sistema y cuarto punto extender su uso a la atención

pretende legalizar legitimar promover y extender la forma de privatización más salvaje que puede sufrir un servicio público eskerrik asko

intervenciones que se realizan en este parlamento cuando usted

en algunas de las oportunidades que hemos tenido de discrepar o de trabajar en diferentes ámbitos me ha acusado en ocasiones

en las residencias y hombre yo ya estoy un poco cansada de que siempre me esté trasladando esas responsabilidades que como usted bien sabe

y yo creo que flaco favor le hace usted con todas esa serie de epítetos exagerados a la hora de calificar lo que está pasando en euskadi

y usted sabe que la evolución del sistema vasco de servicios sociales es un proceso

no ha concluido porque yo no sé de dónde ha sacado usted la información

interinstitucional de servicios sociales y el sujeto de ese proceso en el que participan los tres niveles de las administraciones públicas vascas este órgano conocido como cerrará la evaluación una vez sea escuchado el consejo vasco de servicios sociales como prevé el plan estratégico por lo tanto toda su intervención se ha basado en un borrador en el que en el plan como tengo yo aquí que este es el plan que fue trasladado a los miembros del órgano interinstitucional de servicios sociales

de las cuestiones a modificar y que serán completadas después de haber analizado con detalle por parte de las instituciones y también por parte de las asociaciones que forman parte del sistema vasco de servicios sociales

conocedoras como usted de ese proceso en marcha quiero poner de manifiesto

para el adecuado funcionamiento de las instituciones es fundamental respetar el marco de trabajo que compete a cada una y no interferir en sus procedimientos

que son parte del sistema vasco de servicios sociales y es que usted es parlamentario vasco pero un integrante del oiss

se trata sobre todo de cómo lo hacemos en democracia las formas son muy importantes las formas son claves y definitorias en democracia el respeto institucional y la cortesía parlamentaria son ingredientes básicos para obtener legitimidad política

por la forma en que hacemos las cosas debiera ser común en particular entre las personas que trabajamos en el ámbito de las políticas sociales con personas y para personas por lo que le estoy pidiendo por favor no sensibilidad es lealtad institucional en el oiss se ha producido una obligación incumplida señor rodríguez pero permítame que de esa deslealtad hablemos en el seno de propio oiss el oiss está haciendo ahora mismo su trabajo

dinámica conoce perfectamente un órgano y un trabajo que al igual que el consejo vasco de servicios sociales merecen un respeto

al interferir desde su actual responsabilidad parlamentaria en un proceso no concluido

utiliza torticeramente un borrador interno del futuro informe de evaluación del primer plan estratégico de servicios sociales de la comunidad autónoma del país vasco un borrador únicamente sometido todavía a consideración del oiss antes de remitirlo al consejo vasco de servicios sociales un borrador

de valorar por primera vez y de forma conjunta pero que incluirá multitud de aportaciones de las diferentes instituciones tanto forales como municipales

y en todo caso ya sabe que está trasladando el contenido de una filtración periodística

por mi parte le aseguro que solicitaré comparecer ante esta cámara para dar detalle de la evaluación una vez cerrada para compartir su análisis y su debate le aseguro que estaré encantada de presentarles también el segundo plan estratégico

cuando el proceso de evaluación esté concluido solicitaré comparecer ante esta cámara para presentar la evaluación del primer plan así como para avanzar los contenidos del segundo plan estratégico de servicio sociales y acoger sus aportaciones y sus críticas señor rodríguez

y los diversos agentes sociales que integramos el consejo vasco de servicios sociales con todo no quiero eludir la cuestión principal que usted plantea en su iniciativa respecto al amparo

parece usted funcionar a base de titulares extremos se lo decía al principio hoy los ha calificado como de terrorífico el gobierno está lejos de mantener una posición de privatización o externalización de los servicios sociales y menos extrema como le he dicho no voy a entrar a rebatir ningún dato que usted extrae de una filtración de un primer borrador parcial de un trabajo interinstitucional en curso pero sí le voy a señalar dos cuestiones de fondo relacionados en primer lugar

la iniciativa privada social o sea las organizaciones del tercer sector

constituye un proceso de publificación e internacionalización de servicios más si cabe en el marco de una ley que establece un catálogo amplio de prestaciones y de servicios

un proceso opuesto a la privatización o externalización de servicios de responsabilidad pública

este modelo mixto de responsabilidad público y cooperación con la iniciativa privada con prevalencia de la iniciativa privada social

y lo haremos con todas las especificaciones que al respecto plantea la propia ley de servicios sociales como no puede ser de otra manera porque se trata de un mandato de esta propia cámara un mandato que además resulta plenamente coherente con el modelo de sociedad y los principios y valores que defendemos

la prestación económica vinculada al servicio tanto en nuestra ley de servicios sociales como en la de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia aunque la denomine cheque servicio no se concibe como tal

es empoderar a la persona usuaria de modo que ella sea quien decida cómo responder a esa necesidad

siendo el mercado una alternativa al desarrollo de servicios de responsabilidad pública y de ningún modo

responden a esta filosofía ni en la ley vasca de servicios sociales ni en la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia

se prevé en la ley como una herramienta para consolidar la responsabilidad pública en un escenario de necesidades crecientes y de derecho subjetivo

el acceso a la prestación o servicio del catálogo al que tiene derecho de la persona usuaria por tanto

implica que se reconoce un derecho a un servicio o prestación del catálogo del sistema vasco de servicios sociales que la prestación económica está también garantizada que tiene un alcance temporal mientras alcanza la cobertura suficiente y por tanto está condicionado a la imposibilidad de garantizar temporalmente el acceso al servicio vasco de servicios sociales se trata por tanto de un instrumento que el legislador consideró necesario para desplegar el sistema vasco de servicios sociales

y de la misma manera que se definió el sistema vasco de servicios sociales como un sistema mixto esto viene recogido en la ley de servicios sociales es decir

servicios y equipamientos de titularidad pública y de titularidad privada concertada eskerrik asko artolazabal

lehendakari andrea en primer lugar quiero mostrar mi alegría mi alegría porque es usted capaz de sentir vergüenza es usted capaz de sentir vergüenza parece que le dan vergüenza mis declaraciones o mis discursos en esta tribuna por cierto le invito a que mire las actas y me diga cuándo

le invito a que saque las actas la única persona que ha hablado durante los debates y una entrevista pública de los muertos de las residencia fue usted para restarle relevancia a

por lo tanto yo nunca la he responsabilizado de los muertos

hemos hecho propuestas diciendo podríamos haber evitado con determinadas medidas la propagación del virus en esas residencias y le invito sobre todo a que escuche la intervención que se realizó en torno a la propuesta de resolución presentada por euskal herria bildu y defendida por mí

colectivo colectivo vergüenza debía sentir por otro tipo de actuaciones

usted dice que sí lo desea mire

hay que hacer una reflexión importante es decir lo que la radiografía la radiografía de lo ocurrido estos últimos siete años que por cierto podíamos haber tenido la radiografía del año dos mil dieciséis pero ustedes no hicieron la evaluación intermedia por motivos que desconocemos todavía una estructura que tenía que ser complementaria y temporal se ha convertido

y todo esto que está ocurriendo no puede ocurrir no puede ocurrir

y le molesta a usted y a su departamento y a su gobierno que haya un debate público

sobre hacia dónde quiere usted entre otras personas dirigir el sistema vasco de servicios sociales

por qué le molesta que salgan los datos porque la radiografía es muy clara un sector público una red pública de responsabilidad pública menguante en favor de una de cheque servicios que usted siendo diputada foral en araba durante dos años impulsó a sabiendas de sus gravísimas consecuencias de sus gravísimas consecuencias y de eso sí que le acuso y de eso sí que le acuso

dice un proverbio árabe que eres esclavo de tus palabras

dueña de sus silencios no me ha respondido a lo que le estaba diciendo no me ha respondido si usted pretende legitimar mediante lo ocurrido en contra de la ley que usted misma ha recordado

y es más en el plan estratégico que ha sacado que paso a leerle

dice claramente en todo caso es necesario explicitar claramente que se trata de dos supuestos diferentes que a partir del veinticinco de diciembre de dos mil dieciséis las ayudas económicas individuales no deben concederse y que las plazas asignadas por la prestación económica vinculada al servicio en dos mil once debieran tender a convertirse en plazas en servicios integrados en el sistema vasco de servicios sociales plazas ordinarias

este era el mandato del plan estratégico acorde con la ley que nos ha leído y la asunción de la prestación

entonces se abre la puerta a utilizar de forma

y en base a reducir la cobertura del sistema público porque los datos como decía son claros en su diagnóstico aparte de esas apuestas qué buen instrumento ahora lo utilizaremos para atender a las personas en riesgo de exclusión y a las personas

extremadamente grave extremadamente grave dice su diagnóstico

no es cierto cinco mil seiscientos sesenta y cinco de ellas dos mil setecientos cuarenta y seis

el cincuenta por ciento de esas plazas que dice su evaluación que se han creado y que por tanto legitiman el proceso de privatización de estos últimos siete años ni siquiera existe

no sean sujetos de derecho y los convierta en consumidores hablando de calificativos me parece indecente impúdico deshonesto inmoral procaz desvergonzado

sucio quiere que siga con más sinónimos eskerrik asko rodriguez jauna

mi labor la de este gobierno y le repito que no voy a hablar de la evaluación porque esta evaluación a la que usted se ha referido es un borrador

previo a su traslado al consejo vasco de servicios sociales trece de noviembre de dos mil veinte

que esta evaluación esté aprobada que tenga todas las aportaciones

en el órgano interinstitucional de servicios sociales solicitaré a esta cámara mi comparecencia voluntaria para dar cuenta de todas cuestiones que usted ha ido relatando de una forma sesgada e interesada para de alguna forma desacreditar el sistema vasco de servicios sociales nuestra evaluación va a ser crítica por supuesto y aquí aparecen los datos no yo no quiero esconder ningún dato yo no tengo

para saber realmente en qué situación estamos y que cuando no tengamos las cosas bien realizadas realizar aquellas iniciativas para seguir mejorando

pero también va a ser crítica pero es que usted solamente lo ve por la parte negativa y con esa crítica feroz que ha trasladado en esta intervención

esta cámara cuando definió la arquitectura vasca de los servicios sociales como un sistema integrado por prestaciones por servicios y por equipamientos de titularidad lo hizo

este parlamento nuevamente consideró que la mejor manera de promover y proveer y garantizar en el ámbito de la comunidad autónoma el derecho a las prestaciones era

y si usted lo que quiere es cambiar el modelo lo que tendrá que hacer es modificar esa ley

usted participó en la elaboración del primer plan en ese plan se incluían las pep las ayudas individuales como plazas a la hora

y realizar las proyecciones a dos mil dieciséis yo no le estoy contando nada que usted no supiera usted y yo fuimos diputados forales y sabemos perfectamente cuáles son los entresijos de la cartera del mapa y del plan estratégico en el año dos mil once había peps

está previsto y está tasado en la ley y también se prevé como le digo en el plan estratégico y no es por casualidad

que en este legislativo consideró que este era un instrumento necesario para poder responder a las necesidades crecientes en un escenario de derecho subjetivo

y por tanto lo que hicimos fue utilizar estas prestaciones para cumplir con ese derecho subjetivo que tenían las personas

de verdad quiero tener un debate sosegado con usted y yo quiero tener acuerdos si puedo con usted pero parece que no es posible

si tenemos ese objetivo común de mejorar los servicios sociales en euskadi

esa revisión previa bueno su modelo y el mío no es el mismo eso ya lo sabemos pero tenemos que llegar a un acuerdo si queremos seguir avanzando

estéril y negativa que por varias razones además yo no la comparto

lo importante no es mirar a la naturaleza jurídica público privada sino lo realmente importante es mirar a la finalidad

si no hubiesemos sido capaces de superar ese estéril debate entre

euskadi es hoy lo que es por el papel capital que ha desempeñado la iniciativa social y también por su rico capital social y si todo hubiese quedado reducido a esa

en este país no habría mucha serie de recursos ni cooperativas ni ikastolas
no contaríamos con tercer sector eskerrik asko artolazabal andrea

señora artolazabal como responsable de derechos humanos del gobierno vasco cómo valora el proyecto que está realizando la empresa caf en territorios ocupados palestinos eskerrik asko

de las empresas vascas es un elemento para nosotros indispensable de cara a la sostenibilidad en un mundo global no la sostenibilidad quiere decir riqueza y quiere decir también empleo

uno de los pilares de la política económica de las administraciones vascas

de internacionalización del tejido empresarial vasco la empresa a la que hace usted

tiene un efecto multiplicador en términos de riqueza y de empleo en las empresas y agentes de su entorno

y la administración vasca acordó participar en el accionariado de la compañía con el objetivo de garantizar su arraigo en euskadi fruto de la excelencia de su actividad empresarial caf ha resultado adjudicataria de licitaciones para la construcción de líneas de metro de trenes o tranvías en casi una treintena de países permítame que enumere este listado de países

finlandia suecia estonia noruega alemania países bajos reino unido irlanda bélgica portugal italia argelia túnez china

india turquía arabia saudí estados unidos méxico colombia venezuela ecuador chile argentina brasil y australia israel es un país que se añade a esta larga lista

vuelvo a subrayar el compromiso del gobierno con la internacionalización de nuestras empresas en general y de las empresas tractoras de referencia en particular

salvo que medien actuaciones contrarias al derecho internacional y además es claro

eskerrik asko me esperaba algún tipo de respuesta que no me hubiera dado ya arantza tapia o pedro azpiazu en las preguntas que les he realizado el proyecto se ganó es un proyecto que parece ser un simple tranvía pero que lo único que hace es conectar colonias ilegales ocupadas por parte del estado de sionista del estado de israel y además caf no contenta solo con hacer este proyecto va y

israelí que se dedica precisamente a transportar colonos entre sus colonias como decía ilegalmente

unidas y la respuesta es que no tenía ningún tipo de competencia que este proyecto no es discriminatorio y que colaborar con la ocupación

conclusión mía es legal y según lo que usted acaba de decir también es legal según el gobierno vasco el problema lejos de tener competencias es no tener opinión no ser coherente no ser coherente con el compromiso ciento cinco de su programa de gobierno

ser copartícipe de la obra es ser copartícipe por tanto de la ocupación que está realizando y de lo que está al servicio esta obra

uno coma veintisiete por ciento de las acciones de caf supuestamente para mantener arraigo pero en todas las respuestas de la señora tapia

esas acciones no sirven absolutamente para nada y está por escrito porque no sirven ni siquiera para hablar con la empresa señora artolazabal de qué sirve financiar

históricamente que trabaje con los desplazados precisamente por este tipo de obras porque este tranvía si no usted lo sabe se lo puedo entregar después está desplazando a miles de palestinos y de palestinas de sus viviendas además para hacer especulación urbanística en un territorio que es suyo de qué sirve financiar a la si luego colaboramos con quien está ocupando su

si luego colaboramos con quien está desarrollando esas vulneraciones de los derechos humanos por acción o

de no colaborar con ninguna acción que perpetúe las vulneraciones de derechos humanos no lo digo yo según un informe de la propia naciones unidas está violando el artículo cuarenta y nueve de la cuarto convención de ginebra que dice que el poder ocupante no puede aportar o transferir población hacia el territorio ocupado y es lo que está haciendo

unidas que dice que las fronteras actuales y de ese muro no tienen validez

internacional o van contra la corte internacional de justicia que declara que los estados euskadi es parte de un estado tienen obligación de no reconocer ni colaborar

y que tiene la obligación de no prestar ayuda ni asistencia para el mantenimiento de la situación creada y que la propia unión europea dice que las ocupaciones son ilegales y un obstáculo

de derechos humanos de naciones unidas y hay una solicitud su empresa socia

que colaboran con la ocupación israelí caf tiene bastantes boletos comprados para entrar dentro de eso de esa lista y nosotros lo hacemos además de una defensa de caf y del mantenimiento del empleo de caf y le estamos diciendo desde hace más de un año y medio que se están metiendo en un tremendo

israel es un estado reconocido por la comunidad internacional

organización de naciones unidas ciento sesenta y tres le reconocen por tanto nueve de cada diez ni naciones unidas ni la unión europea han impuesto sanción alguna al estado de israel

ni en la dimensión internacional ni en la europea para la realización de actividades contractuales por parte de las empresas

ninguna convención ni el propio derecho internacional prohíben la construcción de infraestructuras como la que nos ocupa orientada a la prestación de un servicio público de transporte no discriminatorio el propio presidente de la compañía vasca ha sostenido que tal y como es norma habitual

análisis que ha confirmado el cumplimiento de los estándares necesarios y por tanto no es una actividad ilegal como usted afirma

no dude usted de nuestro compromiso y para muestra un botón usted lo ha dicho dieciséis millónes de euros este año pasado

nosotros sabe que desde el gobierno vasco vamos a seguir apoyando al pueblo palestino

jauna zurea da hitza sí señora artolazabal hace unas semanas

en la calle sin poder hacer uso de los recursos habilitados para estas personas

usted hizo unas declaraciones públicas en relación con la posibilidad de acceso de estas personas a estos recursos básicamente afirmando que no cumplían los requisitos de acceso y que

textualmente al uso de estos recursos a sabiendas de la falta de cumplimiento de estas personas de los requisitos necesarios me gustaría

sentarles estas palabras a los voluntarios y voluntarias que dedican su tiempo y su esfuerzo por guiar a los migrantes en tránsito a los recursos habilitados en irun y a su vez también me gustaría que hiciese una valoración respecto a los recursos existentes

del gobierno vasco en irun en relación con la dramática situación de los migrantes en tránsito eskerrik asko soto jauna erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza
eskerrik asko mahaiburu andrea también me gustaría que le preguntaran a la gente de cruz roja que está en el recurso de irun qué les parece cuando les ponen ahí a las personas sin saber y sin tener los derechos bueno derechos no sé

a la hora de su acogimiento en esos recursos usted sabe que las responsabilidades

del ejecutivo del que su partido forma parte permítame que le detalle el papel complementario que las instituciones vascas asumimos solidariamente para ayudar a migrantes en tránsito además sabe de la voluntad y del ofrecimiento que nosotros hemos hecho para acoger a esas personas que también están en canarias ante una situación muy complicada y por tanto creo que poner en duda la solidaridad y el compromiso del gobierno vasco con las personas que peor lo están pasando

muy claro que el fenómeno de la migración es un fenómeno estructural y que por tanto tenemos que dar una solución global y tenemos que integrar y saber integrar esos flujos migratorios y esa diversidad cultural desde que se abrió el recurso en irun en el año dos mil dieciocho han pasado por ese recurso veintiuno mil doscientos setenta y uno personas casi diez mil personas están inmersas en un proceso migratorio han sido acogidas

por el recurso de irun en numerosas ocasiones hemos realizado excepciones en los criterios de acceso para no dejar en situación de calle a personas especialmente vulnerables cuando se han visto cerradas las fronteras cuando se ha limitado la movilidad siempre

generamos en el verano de dos mil dieciocho un plan de contingencia que hemos adaptado a la situación de pandemia y cuando los requisitos y cuando las situaciones han sido hemos podido hemos flexibilizado

este dispositivo no está dirigido a personas solicitantes de asilo ni a personas que hayan iniciado trámites de solicitud de protección internacional tampoco a personas que llevan residiendo

migrantes tienen otros recursos a su disposición por nuestra parte mantendremos nuestra

en la atención integral a las diferentes tipologías de migrantes eskerrik asko artolazabal andrea

de reconocer que sus declaraciones en relación con la labor que hacen los voluntarios y voluntarias de la red de acogida es de reconocer y de valorar positivamente hablar de incitaciones en relación con el incumplimiento de requisitos en el acceso

que no flexibilizan su acceso y que por tanto suponen que esas personas durmieran en esa calle así como también mujeres que esos mismos días que aún en la calle porque detenidas por la policía nacional

afirmar perdón para redirigirles o derivarles a recursos existentes

existen huellas huellas de color en estos momentos en la ciudad

en la ciudad de irun si estas huellas de color así como los propios voluntarios no existieran

de la existencia de estos recursos transitorios resulta preocupante que ante una situación de cierre de fronteras

de movilidad existentes a su vez con los requisitos perdón

en relación con la flexibilización de los requisitos en los accesos a estos recursos el gobierno vasco

lo hayan hecho porque sí en casos puntuales probablemente lo haya hecho la cruz roja una vez

de los recintos pertinentes en cualquier caso la situación de los migrantes en tránsito en irun es vergonzosa ya sea porque incluso

vídeos y fotografías por parte de la policía francesa deteniendo discriminatoriamente a migrantes en tránsito y devolviéndolos

y no ha habido en este sentido las declaraciones y las denuncias contundentes por parte del gobierno vasco por lo que supone

por otro lado consideramos que hace falta un sistema de acogida un sistema de acogida para las personas que acuden a euskadi que son

acoger y por otro lado en relación

de la red de acogida han hecho una solicitud para poder reunirse con usted y con su equipo para valorar la situación

le pido que por favor extienda su mano y que se reúna con ellos y con ellas para valorar la situación y no solo derive la responsabilidad a conversaciones

proyectos de cara a poder atender las necesidades de cualquier colectivo y también de las personas migrantes cruz roja

de migraciones en la atención a las personas migrantes en tránsito y por tanto

por supuesto que nosotros estamos de acuerdo en un sistema de acogida vasco en eso ya estamos trabajando existe un plan interinstitucional en el que las diferentes instituciones organismos

asociaciones trabajamos en dar acogida y proporcionar servicios a esas personas que lo necesitan en función de su situación asilados gente que está en tránsito

integrarse en nuestra sociedad lo que pasa es que no puede ser que se nos pongan

de irún de cruz roja personas que saben perfectamente que ese recurso no está destinado para ellas sí que hemos hecho muchas derivaciones de colectivos de personas migrantes

existe ya ese protocolo y ese circuito establecido y a nosotros lo que creo que poco

es que tengamos que asistir a situaciones que a veces se utilizan de una forma

para intentar desacreditar el trabajo de las instituciones yo creo realmente que si la asociación de irún quiere
trabajar conmigo quiere disponer de nuestras o sus inquietudes eskerrik asko artolazabal andrea